en un tema tan opaco como el sistema eléctrico algo habremos conseguido con este grupo de trabajo con esta ponencia si logramos que la ciudadanía

sepa cuál es el coste verdadero de esa acción algo habremos logrado

eléctrica del estado español es para pagar el déficit de tarifa o que ese déficit de tarifa

millónes de euros está provocado por las primas a las renovables ante falacias de tal tamaño la mejor herramienta para luchar contra ellas es la información

la información sobre cuál es la realidad de ese déficit de tarifa que no es la diferencia entre los costes reales de una producción eléctrica y los ingresos que existen

asumidos en beneficio de unas cuantas empresas decisiones políticas

de muchos años por una serie de partidos políticos

las primas al carbón estatal el mantenimiento de una red de transporte ineficiente y sí también las primas a las renovables

en todo el mundo se preconiza una apuesta por las renovables como la herramienta más eficaz de lucha contra el cambio climático

para que esas energías renovables para que esos modos de producción renovables sean competitivos con otras fuentes de producción mucho más contaminantes como la nuclear

hay que primarla porque durante años los costes medioambientales de la nuclear y el carbón para que esas fuentes de producción sean competitivas

de la que hemos hablado en infinidad de ocasiones y a la que por fin llega la hora de dar respuesta aunque es justo reconocer que quizás es un tema que debiéramos haber abordado todos antes

e intenso que puede sustanciarse y se sustanciará en la ponencia que desde eh bildu plantean en su iniciativa original pero es importante señalar

el sistema de producción y la apuesta o no por las renovables son responsabilidad competencia y trabajo de todas las administraciones desde la local hasta la central

actual el gobierno de españa liderado por el partido popular no lo está poniendo fácil no hace más que poner trabas en el camino y enfrentar a los sectores implicados las energías renovables en opinión de los socialistas debiera ser la apuesta de cada uno de los diferentes gobiernos las entendemos como el futuro en el suministro energético y en el desarrollo de un nuevo sistema de producción

porque es verdad que debemos debatir pero también es verdad que en esa ponencia deberemos

y afrontar el verdadero debate sobre las energías renovables

pero luego cuando llegan los proyectos no se pueden crear plataformas y plataformas en contra de las mismas como ya ha ocurrido por ejemplo

esa afirmación la afirmación en defensa de las energías renovables no la hace únicamente el grupo socialista la mayoría de la sociedad vasca tal y como dice la última encuesta

la solar la eólica y la hidráulica por tanto se hace evidente la necesidad de dar un giro intenso

así como la introducción de cambios valientes debemos avanzar con decisión

los socialistas apostamos tal y como dijimos en nuestro programa electoral

para lograr la autosuficiencia energética y el reconocimiento del derecho de toda la ciudadanía a generarla en este futuro contexto es importante el impulso de las redes eléctricas inteligentes que permitan a los usuarios volcar dicha energía a la red y hacer un uso más sostenible de la misma ante la preocupación cada día más creciente de la sociedad en torno a este tema y teniendo en cuenta que la energía es un eje principal de las políticas prioritarias

el gobierno liderado por el lehendakari lópez en diciembre de dos mil once presentó la estrategia energética de euskadi

una estrategia de un amplio consenso político que fue debatida en el parlamento vasco

de un importante proceso de elaboración de participación y de cooperación el documento pretendía y pretende marcar la política energética durante la próxima década

que esta estrategia debiera ser el documento base a partir del cual comenzar a trabajar entendiendo como es verdad que las nuevas medidas planteadas por el gobierno del señor rajoy

la apuesta decidida por el ahorro energético el impulso de las energías renovables

la puesta en marcha de estos ejes dará como resultado un sistema energético más sostenible

se incrementa el uso de las renovables y se configura ese mix energético y eléctrico más equilibrado que siempre buscamos y defendemos el sector de la energía da empleo hasta hace un año según los últimos datos a veinticuatro mil cuatrocientos personas repartidas en más de trescientos cincuenta empresas su facturación en euskadi

sesenta y nueve millónes de euros e inviertan ciento ochenta y ocho millónes

las empresas del sector energético cuentan en euskadi con mil novecientos empleados

y la necesidad de abordar un debate que lleva demasiados años paralizado y según los datos facilitados por el propio gobierno del señor urkullu en dos mil doce euskadi produjo

en electricidad la producción autóctona suministró el cincuenta y seis por ciento de la demanda siendo el veintiuno por ciento la cogeneración y las renovables y siendo el cuarenta y cuatro por ciento restante importaciones de electricidad por lo tanto con estos datos lo que queda claro es que queda mucho por hacer y entendemos

será el foro en el que plantear alternativas y políticas concretas siendo valientes y por fin tomando decisiones de futuro para el país por tanto poco más que añadir
porque lo que sí que es cierto es que en el tema de la energía queda casi todo por hacer muchas gracias eskerrik asko rojo andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna

a todas y a todos a falta de conocer el contenido

o han firmado el grupo socialista y el grupo eh bildu parece evidente que

transaccional porque al parecer el grupo nacionalistas vascos va a votar también a favor de ello por lo tanto se creará esta ponencia una ponencia en la que se tratarán asuntos que nosotros nos parecen ciertamente importantes

no sabemos si finalmente podremos estar porque upyd

donde nos gustaría en todo caso espero que en esa ponencia se traten asuntos de interés y se traten también asuntos que a continuación

me parece un tema ciertamente importante la política energética es uno de los fundamentos de la política económica general de cualquier país desarrollado

y por tanto de la competitividad económica los costes energéticos de la red de transportes también tienen gran importancia económica y medioambiental

una política energética orientada a mejorar la capacidad económica del país tendrá como primer objetivo reducir en lo posible la factura energética mediante el impulso de estrategias

en el caso de españa se debe potenciar el empleo de las fuentes renovables de energía eléctrica dependientes del sol la atmósfera

finalmente la producción y consumo de energía debe tener muy en cuenta el impacto ecológico que produce tratando de minimizarlo y adoptando medidas de sostenibilidad

y del deterioro medioambiental en síntesis la política energética debe perseguir mejorar la competitividad de la economía especialmente en la industria y el transporte buscando un suministro seguro

mejorar la autonomía de la producción de energía y el ahorro y eficiencia en el consumo y optimizar la sostenibilidad medioambiental reduciendo el impacto ecológico se trata de que la factura energética no suponga un obstáculo al desarrollo de la economía productiva

o tenga un coste inasumible ni provoque daños medioambientales intolerables una política semejante solo puede ser una estrategia de estado

adaptable a los cambios tecnológicos económicos y geoestratégicos la planificación y regulación del sector eléctrico es particularmente importante

el transporte ferroviario y el consumo doméstico la regulación del sistema eléctrico debe formar parte de un plan nacional de energía dentro de la normativa europea una decisión fundamental en este campo es la constitución de un mix energético

el mix debe combinar las diversas fuentes de energía eléctrica disponibles según los criterios de competitividad seguridad del suministro autonomía y sostenibilidad

un mercado eléctrico regulado transparente y liberalizado donde la formación de precios sea pública y la competencia entre empresas productoras equitativa al igual que debe existir competencia real entre los comercializadores del consumidor sin embargo la política energética seguida por los sucesivos gobiernos de la democracia española no se ha ajustado a estos objetivos y criterios ha sido

por intereses espurios de determinados sectores energéticos por intereses políticos de partido y por incongruencias estratégicas produciendo fenómenos como el déficit de tarifa los bandazos en las primas a las renovables

la eficiencia y la inversión y la opacidad generalizada del mercado eléctrico la mala política energética y en concreto eléctrica ha perjudicado

la pésima política energética de los sucesivos gobiernos españoles ha agravado la crisis económica y complicado las perspectivas de recuperación

disminuir drásticamente la inversión privada doméstica e internacional en el sector eléctrico y crear una situación

otra consecuencia indeseable de esta política errática es el inexplicable maltrato dado a los nuevos sistemas de generación y consumo como el autoconsumo con balance neto en relación al déficit de tarifa tarifario a principios de año

millónes de euros todas las medidas aprobadas para reducir primero y eliminar luego el déficit de tarifa han fracasado por supuesto son los contribuyentes y consumidores los que acabarán los que acabaremos financiando el déficit vía impuestos y tarifa eléctrica tarifario tiene su origen en una decisión política diferir el pago del precio real de la electricidad semejante decisión tomada por

solo se explica por la combinación espuria de intereses electorales de partido y de connivencia del poder político con el de las principales empresas eléctricas la lógica del déficit tarifario fue mantenida después por los gobiernos presididos por

de déficit de tarifa es una curiosa mezcla de populismo y oligopolio buscan no trasladar directamente los costos al pequeño consumidor doméstico y a la vez asegurar sus ingresos a las grandes compañías mediante la garantía pública

este desequilibrio fue empeorado en los años de bonanza con una política fiscal irresponsable de primas a las energías renovables que ascendieron a una cifra muy superior a la prevista por el atractivo de sus grandes ventajas fiscales

requiere no solo de medidas técnicas y financieras correctoras sino de un cambio a fondo de la política energética del sector eléctrico que debería incluir al menos

auditoría externa de la formación de precios de la electricidad liberalización del mercado eléctrico para conseguir un sistema de formación de precios competitivo

no tenemos reforma en profundidad de las normas actuales que regulan el sector eléctrico potenciar la innovación la eficiencia y el ahorro energético y el apoyo a las fuentes de energía más competitivas y eficientes como la cogeneración

con balance neto resolver en las instituciones europeas y españolas comunidades autónomas y ayuntamientos los problemas de conexión eléctrica con europa

energética y elaborar un plan energético nacional que debería contar con una serie de características que

han sido las que nosotros hemos incluido en nuestra enmienda de totalidad

a lo que nosotros consideramos fundamental la puesta en marcha de un plan energético nacional

que esta enmienda nuestra que ya es extensa podría haberlo sido mucho más si hubiéramos incluido todos los argumentos que estoy exponiendo en mi intervención en todo caso habrá tiempo aunque no sabemos si nosotros podremos estar de debatir todos estos asuntos y otros muchos en esta ponencia que se pondrá

como decía el proyecto de ley la ley del sector eléctrico lejos de ir en esta dirección consagra y profundiza en las medidas ya aprobadas y como definitiva demostración del fracaso sin paliativos de la política energética ha conseguido en pocos años una de las facturas eléctricas más caras de europa para los consumidores domésticos sin cambios profundos en la regulación del sector eléctrico

no se conseguirá otra cosa que su enquistamiento transformado en un alza general del precio de la energía eléctrica y en consecuencia menor

y mayor carestía del coste de la vida para una población ya muy castigada por la crisis el conservadurismo en la regulación de este sector no tiene otra explicación

modelo de connivencia entre empresas y élites políticas en el marco de un sistema intervenido por el estado y solo superficialmente liberalizado espero y deseo que en esa ponencia que se va a poner en marcha todos estos asuntos puedan ser tratados nosotros trataremos de estar porque ya digo que es un asunto ciertamente importante y en todo caso si nosotros no podemos estar espero que ustedes traten todos estos asuntos sin olvidar que el futuro es europa y las políticas comunitarias

poder alcanzar una política energética en el marco de la unión europea porque creo que sería lo que más nos interesaría a todos y que pudieran incluirse

gracias señora presidenta buenos días señorías el modelo energético que viene desarrollándose en euskadi

dentro de la estrategia energética dos mil veinte está basado en los criterios establecidos en el parlamento vasco las directrices energéticas y de desarrollo sostenible

así como los condicionantes económicos sociales y territoriales de euskadi

desarrollo de un sistema energético orientado a la consecución de una economía baja en carbono garantía de suministro energético para los distintos sectores de la economía

y del origen de las energías primarias potenciación al máximo

despliegue de las energías renovables compatible con la preservación del medio natural energía eólica energía solar

energía de la biomasa y energía geotérmica potenciación de estrategias de gestión de la demanda eléctrica que actúen al mismo tiempo de fuerza directriz

en materia de almacenamiento de energía en sus diferentes formas

potenciación del gas como energía de transición entre el viejo modelo energético basado en gran medida en los combustibles fósiles y el nuevo modelo

con las energías renovables potenciación de la movilidad sostenible con especial apoyo al desarrollo e implantación del ferrocarril y de los vehículos eléctricos y por último utilización de la política energética

y suministro de componentes equipos y servicios energéticos con la finalidad de dar cumplimiento a estos objetivos se han marcado un conjunto amplio

las energías renovables y las energías más limpias como ustedes bien conocen todos esos principios y objetivos están en la estrategia energética de euskadi

y también en las veintinueve resoluciones que se aprobaron en relación con la comunicación relativa a dicha estrategia porque señorías la estrategia energética

aborda las específicas necesidades energéticas de nuestra comunidad

y requerimientos de ámbito nacional y europeo y contempla una política institucional comprometida y ejemplarizante con tres objetivos clave el ahorro un mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y el fortalecimiento del tejido tecnológico industrial autóctono las consecuencias de estos objetivos

la mejora de la eficiencia energética así como trabajar en la consolidación de las infraestructuras que garanticen la calidad y la seguridad del suministro sin comprometer la sostenibilidad económica y ambiental qué propone bildu ahora hacer tabla rasa de todo esto y ponernos a todos a pensar qué

basado en la producción descentralizada renovable en el ahorro y la eficiencia energética para posibilitar una completa soberanía energética

habitual sino desde mi punto de vista supone no tener en cuenta años de trabajo del gobierno vasco y de este parlamento de españa y de la unión europea

llevan impulsando una estrategia energética consensuada

de las distintas fuerzas políticas pero sí aprobada por la mayoría de lo representantes de los ciudadanos para satisfacer nuestra demanda energética porque

energética de euskadi dos mil veinte en junio del dos mil doce hace bien poco no se conocían las necesidades energéticas del país vasco ni las de sus empresas y sus ciudadanos ni sus posibilidades

es que fue un trabajo alejado de la realidad es que los grupos no presentaron propuestas pues se aprobó

es un documento de futuro con una importante visión de país y que es importante que salga respaldada por un amplio acuerdo político para que a partir de ahora tenga una garantía de futuro más allá de una legislatura ya que esa estrategia

amplio complejo con objetivo y con metas de futuro y la portavoz del pnv

propuestas para los próximos años porque realmente decía creemos que este documento recoge ya las líneas establecidas y definidas

por gobiernos anteriores y sobre los cuales se consiguió un importante consenso prácticamente unánime por lo tanto señorías

y desde nuestro grupo valoramos el trabajo realizado en su día por el parlamento y por tanto no consideramos necesaria la propuesta que nos presentan

cambiar de arriba a abajo el modelo energético vasco muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

o miedo a ir a una ponencia a una comisión

un plan que fue ampliamente consensuado en este parlamento pero tal y como han dicho los portavoces del

encargado de cambiar las condiciones y parece que hay miedo a que se pueda

entonces más que una negativa a una ponencia que es lo que nos ha presentado la señora iturmendi

ganas de no sentarse a discutir el tema en fin gure aldetik ponentzia hau bidezkoa ikusten dugu

un poco extraño escuchar la defensa que ha hecho la señora iturmendi de la estrategia energética dos mil veinte que se aprobó en la legislatura pasada porque el debate que tuvimos en este parlamento sobre esa estrategia fue más bien escasito

grupos pedimos que se trajera aquí una estrategia ya aprobada por el gobierno y de hecho del debate que hubo en comisión de esa estrategia todas las propuestas de resolución que se llegaron a aprobar ni siquiera hoy en día en el texto que está colgado en la página de eve

por lo tanto no es que fuera una estrategia que se caracterizara especialmente por un debate político intenso y muchísimo menos un debate social que es algo que reclamamos

el debate energético y en este caso el debate energético eléctrico

energética en esa estrategia energética cuando existe una directiva del año dos mil nueve la conocida como directiva de la unión europea que obliga a los estados para el año dos mil veinte entre otras cosas a que la producción energética total sea un veinte por ciento renovable pues en esta estrategia se reconocía que simplemente se iba a llegar al diecisiete por ciento de la comunidad autónoma vasca

y diecisiete por ciento en el año dos mil veinte que tampoco es una exigencia

yo pongo en duda verdaderamente que vayamos a llegar a ese diecisiete por ciento

que obliga la unión europea sobre esos temas queremos discutir por qué por qué no estamos produciendo en energías renovables cuando en todos los documentos

de cambio climático y de temas energéticos se habla de lo estratégico que es el sector

un país como españa que anuncia su turismo de sol y playa en estos momentos tiene menos producción fotovoltaica que alemania esos temas

de cinco empresas concretas en su día por la nuclear y el carbón y hoy en día por el gas y por los ciclos combinados

en esa ponencia en definitiva lo que pretendemos sobre todo

vital para muchas personas porque después de la reforma o no reforma mejor dicho del sistema eléctrico que ha hecho el gobierno

supone todo un reto por no decir para algunas empresas que abrir la persiana sabiendo el coste que va a tener el consumo de energía eléctrica en esa empresa

un documento aprobado y no hacer nada y creemos que no creemos que

y tenemos que ver desde aquí qué es lo que podemos hacer para cambiar esa situación

gracias presidenta otra vez muy brevemente mire señora iturmendi yo entiendo que venir al parlamento vasco a intentar defender la barbaridad que se está haciendo

tiene su mérito yo reconozco que no siempre es fácil subir a la tribuna para defender algo

si valoramos el trabajo que se hizo en gobiernos anteriores fíjese si lo valoró que era liderado por el señor lópez y que presentó esa estrategia energética que hoy usted pone como modelo y que es lo que debiéramos de hacer en el país vasco yo he planteado que ese podría el documento base a partir del cual poder empezar a trabajar pero usted deberá reconocer que con las reformas y con las

ese documento hay que actualizarlo y poner sobre la mesa los cambios que afectan a la política energética marcada en esa estrategia pero le diré más quizás debiéramos hacernos una pregunta mucho más básica que es preguntarnos si entendemos

que da respuesta a una demanda fundamental de los ciudadanos si entendemos que la energía es un servicio para el ciudadano y por tanto tiene un carácter de básico quizás nos debiéramos preguntar si esta energía debe estar en manos públicas o debe estar en manos de media docena

que no hacen más que ganar dinero a cuenta de una explotación acaban pagando los ciudadanos y esa es la diferencia entre lo que piensa

y un partido de izquierdas como el partido socialista que lleva todo lo contrario en su programa electoral porque hace unos días hubo una comparecencia parlamentaria en la comisión de competitividad

de pequeños empresarios que habían apostado por las energías renovables

y que ha acabado arruinando a miles y miles de personas que apostaron por las energías renovables en este caso eran las fotovoltaicas

está claro que las diferencias ideológicas también quedan claras en el tema de la energía por eso señora iturmendi le planteo usted cree que la energía dada la importancia que tiene el servicio público que da a los ciudadanos que son quienes acaban pagándola

eso es lo que queremos debatir dar respuesta y desde luego lo que tenemos claro es que el partido socialista estaba en contra de la energía nuclear y así lo hizo está a favor de las energías renovables es lo que defiende ahí está la estrategia energética dos mil veinte

con esta intensidad esta estrategia energética que desde luego dice en la mayoría de sus ejes lo contrario de los que ustedes defienden en sus programas electorales en algunas cosas

cuando lideran gobiernos sobre todo con mayoría absoluta porque siempre se unen a eso de lo que dicen los representantes de los ciudadanos solo en aquellos lugares donde tienen mayoría absoluta pero
todo cambiará y más vale que cambie nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea mistoak

gracias presidenta yo me preguntaba que qué es lo que ha cambiado en este parlamento

y qué es lo que ha cambiado después de esa defensa ardiente que como dije

de la señora rojo respecto a la estrategia de energía dos mil veinte y

sobre el modelo de producción energética para este país pues que ahora están estos parlamentarios algunos que no estaban concretamente este sí estaba es una posibilidad es una posibilidad ese cambio

y mirando las sesiones de elaboración de la estrategia de las propuestas de resolución

la crisis ya estaba presente lógicamente y así los grupos lo reflejaban en las intervenciones y en las aportaciones tan es así

en esa ponencia establecía y consideraba que era necesario

estrategia energética de euskadi dos mil veinte presente al parlamento vasco en

hacer una revisión una adaptación de esa estrategia energética que dice la señora rojo que defiendo con tanta intensidad porque estaba previsto esto

y esa propuesta del señor olazabal portavoz del grupo popular

y considerando la necesidad de analizar la puesta en marcha los cambios que pudieran surgir fue la primera propuesta de resolución

y claro que la crisis estaba presente en la estrategia energética y claro que gravitaba sobre aquel trabajo por eso nosotros introdujimos esa propuesta de resolución ahora bien

de españa era eso señora rojo era igual eso que es que igual

era necesario constituir una ponencia para hablar de temas

que ya se hablan en este parlamento y qué es lo que ocurre señorías me van a permitir que haga una referencia

que lo padecen aquellos que quieren comenzarlo todo de nuevo con poca seriedad intelectual sin continuidad del proyecto

de un mundo nuevo como si nada anterior hubiera existido antes o no mereciera la pena tenerlo en consideración

muchas gracias eskerrik asko

parlamento y me gusta que esté hoy aquí porque esta proposición no de ley creo que va a tener bastante importancia

los socialistas vascos registramos el día dieciocho de marzo esta proposición no de ley relativa al plan especial contra la pobreza y la exclusión social que ocho meses después debatimos en esta cámara y creo que es muy propicio el debate

del dos mil doce que conocimos en el primer trimestre de este año revela un importante aumento de la pobreza y la exclusión en nuestra comunidad autónoma un

a sus obligaciones y gastos habituales sin que se hubiera superado nunca el trece coma uno por ciento del total

esta proporción se sitúa en el año dos mil doce en el veinticuatro coma cinco por ciento la encuesta revela que hay trescientos treinta y tres mil novecientos ochenta y seis personas en situación de pobreza

y que dos mil noventa personas están sin hogar

sin duda han contribuido a reducir las tasas de exclusión y pobreza en euskadi

por eso insistimos nuevamente que es imprescindible mantener y garantizar las dotaciones económicas necesarias para cubrir la rgi la

además la necesidad de desarrollar políticas específicas centradas en la prevención y en el abordaje de la pobreza y la exclusión social

interinstitucional que permitan coordinar las intervenciones de los diferentes agentes a partir de objetivos de enfoques y de indicadores comunes señorías

decisiones estructurales que atajen las causas del problema

decisiones en todo caso que habrán de contar con un amplio acuerdo social pues en su aplicación han de implicarse las instituciones y la sociedad vasca en su conjunto

y la exclusión social en euskadi vencer la pobreza y la exclusión social ha de ser una causa colectiva

no pueden ser un freno cuando lo que está en juego es el derecho de miles de personas a tener una vida digna la ley doce barra dos mil ocho de cinco de diciembre de los servicios sociales y en lo relativo a los planes especiales en el artículo treinta y nueve recoge que el gobierno vasco podrá elaborar

que pudieran verse afectadas planes integrales para municipios comarcas u otros ámbitos territoriales que por circunstancias especiales precisen de una acción coyuntural a corto y medio plazo además de planes que aborden elementos específicos del sistema en los que desde una perspectiva transversal sea necesario profundizar

de las necesidades a satisfacer los planes especiales una vez aprobados en el consejo de gobierno serán remitidos a efectos informativos a este parlamento

finalmente he de decir que hemos alcanzado un buen acuerdo con todos los grupos de esta cámara a excepción de eh bildu porque

que incorporásemos el primer punto de su enmienda en donde básicamente quieren que rechacemos todo los recortes efectuados en los últimos años

como portavoz socialista entiendo que lo que ellos pretenden incorporar se lo tendrán que convertir en vez de reivindicación en acción y digo esto

está aplicando recortes y a mí me gustaría que en vez

y le digo esto señora blanco y se lo digo desde el respeto porque hace

concretamente donde gobierna bildu han modificado los alquileres de las viviendas sociales

y le voy a decir la modificación va entre un veinticinco y un cuarenta y ocho por ciento han pasado de alquileres de ciento cuarenta euros

una orden del dos mil diez mal y a una moción que presentó el grupo socialista bildu votó en contra entonces cuando ustedes corrijan eso nosotros

y hacer otra y ya es hora de poner un poquito de orden entre todos quiero decir y termino que valoro por lo tanto el acuerdo alcanzado entre todos los grupos que consta de tres puntos el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que en un plazo máximo de cuatro meses y en colaboración con las diputaciones forales y ayuntamientos

elabore impulse y ponga en práctica un plan especial contra la pobreza y la exclusión social para aquellos municipios y comarcas que por circunstancias especiales precisen de una acción coyuntural a corto y medio plazo además el parlamento vasco insta al gobierno vasco a adoptar las medidas necesarias para favorecer la inserción

y en tercer lugar el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que una vez elaborado y aprobado en consejo de gobierno sea presentado en la comisión de empleo políticas sociales y vivienda

de que lanbide el servicio vasco de empleo se va a poner al servicio de los trabajadores de fagor electrodomésticos para que a través de los planes comarcales de empleo

está muy bien señor consejero estoy de acuerdo y en este sentido también le puedo asegurar a usted y al lehendakari y al gobierno

de todas las personas que están perdiendo sus trabajos como consecuencia del cierre de las empresas y en ese sentido también va nuestra proposición no de ley

gracias presidenta hace apenas quince días debatíamos en la comisión correspondiente una iniciativa de upyd

infantil y en esa iniciativa tras discutir esa iniciativa llegamos a una transaccional en la que instábamos al gobierno vasco a elaborar y presentar en el parlamento en el plazo de cuatro meses un plan que recogiera

y la exclusión social y que contemplara de forma especial medidas específicas dirigidas a la prevención y lucha contra la pobreza infantil fue una transaccional firmada

que fue aprobada con la abstención y con ciertas reticencias de los grupos de eh bildu y del grupo nacionalistas vascos y hoy hablamos de esta iniciativa del grupo socialista relativa a la puesta en marcha de un plan especial contra la pobreza y la exclusión social en fin da la sensación que consecuencia de la crisis económica

en los últimos tiempos la pobreza desgraciadamente se abre paso en euskadi se incrementa el desempleo se incrementa

se incrementa el número de familias sin recursos en fin se incrementan situaciones de desigualdad de pobreza y lógicamente ante estas situaciones nuestra obligación es llamar la atención de los poderes públicos y entiendo que es lo que

esta iniciativa del grupo socialista que nosotros desde un principio veíamos con buenos ojos nuestra enmienda de totalidad proponía básicamente añadir el hecho de que este plan especial contra la pobreza y la exclusión social con la participación de las diputaciones forales vascas y de eudel o de los ayuntamientos cosa que por otro lado también recogen las enmiendas de totalidad planteadas por el grupo popular y por el grupo nacionalistas vascos efectivamente son muy preocupantes las cifras que reflejan la encuesta de pobreza

y gastos cotidianos porque refleja crudamente los efectos que está teniendo la crisis en el conjunto de la población incluido sectores que hace unos años ni se podían imaginar que pudieran entrar en una situación de este tipo hay en euskadi más de doscientos dieciocho mil personas que se encuentran con ausencia de bienestar aumentando este indicador

entre dos mil ocho y dos mil doce en el mismo periodo la pobreza

pero es que el porcentaje de las personas que están en riesgo de caer en la pobreza se eleva

de la población vasca el estudio pone en valor como no podía ser de otra manera que el sistema vasco de renta de garantía prestación de vivienda y ayudas de emergencia social están teniendo un impacto muy positivo muy importante para frenar

la pobreza creo que todos nosotros somos conscientes de ese sistema de protección del que disfrutamos pero eso no nos debería caer en la autocomplacencia porque

en riesgo de perder las condiciones básicas de

veíamos razonable la propuesta de que se haga un plan especial contra la pobreza y se ponga en práctica contemplando aquellas zonas y comarcas donde los indicadores son más preocupantes

para toda la comunidad por comarcas y municipios y proponíamos también que se haga con la participación de las diputaciones y los ayuntamientos cosa que obviamente se ha recogido en la enmienda transaccional que obviamente apoyaremos hay datos ciertamente preocupantes

euskadi es cierto que está mejor que la mayoría de las comunidades autónomas españolas

la pobreza se está incrementando en los últimos tiempos y por lo tanto es obligación nuestra exigir al gobierno planes concretos medidas

estas situaciones recientemente leíamos que

sin techo deambulan por euskadi y leíamos también recientemente que casi doscientos cincuenta personas duermen a diario en la calle en las tres capitales vascas en fin

situaciones muy complicadas que debemos enfrentar de la mejor manera posible y lo más unidos posible

transaccional puede servir a corregir estas situaciones nosotros en todo caso así lo esperamos gracias eskerrik asko maneiro jauna

egun on señora sarasua yo no pretendía bajar en este primer turno a replicar pero ya que se ha dirigido usted a mí ni siquiera escucharle le voy a contestar yo también estoy en un ayuntamiento

también veo muchas incongruencias y muchas incoherencias en su partido todos los días entonces

pero me parece que no es el momento ni el lugar cuando quiera usted hablamos de lo que ocurre en su ayuntamiento y en el mío

hauengatik en la parte dispositiva de la enmienda transada

coyuntural a corto o medio plazo cuáles son los criterios que se van a aplicar para decidir en qué municipios o en qué comarcas hay que hacer ese plan

a criterio de eudel ese plan será un plan con medidas comunes para los municipios o comarcas que lo necesiten o será un plan

esan genuen eta gaur berriro esaten dugu eta hortik gu ez gara mugitu compartimos la preocupación por la realidad social que nos rodea nos preocupa y mucho

de las personas que están en situación de desempleo no cobren prestaciones y además consideramos preocupante la situación de las mujeres desempleadas

doblemente vulnerables muchas familias se encuentran en una situación desesperada porque no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas

esfuerzos en intentar solucionar esta situación que ciertamente está presente en unos municipios y en unas comarcas más que en otros

también conviene recordar que las situaciones de pobreza y exclusión social de las familias las personas de nuestro país están directamente relacionadas con la reforma laboral la misma que provoca más precariedad en las contrataciones

nada beneficiosas para las trabajadoras los trabajadores la misma reforma que permite la reducción de salarios de manera injusta y al hablar de pobreza

actualmente y lo será en un futuro una causa directa de que muchos pensionistas se encuentren en situación

todas ustedes todos ustedes saben que muchos pensionistas tienen que solicitar ayudas sociales para poder cubrir sus necesidades básicas euskal herria bildu lo tiene claro

a que elabore un plan contra la pobreza y la exclusión social lo que debemos hacer es salvaguardar y fortalecer nuestro sistema de protección social

todas estamos en una situación de vulnerabilidad y necesitamos de una política social fuerte protectora e inclusiva que vele por nuestros derechos pero también tenemos muy claro que los agentes sociales y sindicales son especialmente importantes en este sentido y que el gobierno tiene que mantener o debería de mantener un contacto continuo y permanente con ellos para potenciar el marco de la protección social

debatean eta gaur berriro ere esaten dugu y para finalizar es cierto y tengo que agradecer al grupo socialista el grupo proponente que nos pasase la propuesta de transacción

porque como bien ha dicho usted nosotros lo que solicitábamos es que dentro de esa

sozialistak aurkeztutako beste proposamen bat gai honi buruz la encuesta de población y desigualdades sociales nos da una información acerca de la situación de pobreza en la que se encuentran

hogares de la comunidad autónoma del país vasco en estos últimos años se ha incrementado el número de hogares que se encuentran con dificultades para mantener sus niveles de gasto habituales y hacer frente a las necesidades más

importantes tenemos un dato que además hemos conocido recientemente que es donde se ve claramente la incidencia de los efectos de la crisis económica que es en el número de desempleados con el último dato tenemos ciento setenta y ocho mil doscientos sesenta y siete personas

en el paro desempleados en la comunidad autónoma del país vasco si bien es cierto que el ritmo de destrucción de empleo

que están ahí y que obliga a todas las instituciones competentes a adoptar medidas para paliar los efectos

consecuencias de la crisis económica como decía obligan a todos los gobiernos a tomar medidas para paliar los efectos de la misma crisis y para poner las bases

salir cuanto antes de la crisis económica y poder generar empleo ahí tienen que ir dirigidas y ese tiene que ser el objetivo de las distintas que se pongan en marcha cuando vemos la encuesta de pobreza y desigualdades del último año del año dos mil doce los principales aspectos que se resumen en la misma son los siguientes que la crisis económica se traduce en un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a las obligaciones

que aumentan las situaciones de riesgo y pobreza y precariedad ligadas a la insuficiencia de ingresos y que aumentan también las formas de pobreza encubierta para nosotros para el grupo popular sería conveniente realizar un análisis del impacto de las situaciones de riesgo

y también en algunas zonas de mayor riesgo las zonas que puedan estar afectadas y los grupos más afectados por la pobreza y precariedad

en comarcas especialmente afectadas que llevará a que se pongan en marcha planes específicos planes comarcales de empleo

a situaciones y a malas noticias como las que hemos conocido estos días

de fagor hay que destacar también los avances que se han experimentado en los últimos años en el sistema de protección social y la cobertura del mismo que hace que las tasas de pobreza y precariedad

en este sentido hay que resaltar concretamente el sistema de prestaciones de protección social que se plasma en el sistema de prestaciones

y el efecto que tienen la aplicación de las distintas políticas sociales para nosotros con un doble objetivo muy claro garantizar la cobertura económica de estas personas de las personas que lo están pasando mal

se destinan realmente a las personas que lo necesitan pero decía que con un doble objetivo

dar a estas personas oportunidades de salir de esa situación con formación con planes de inclusión específicos orientados a la misma nosotros proponíamos en nuestra enmienda de transacción dos aspectos fundamentales perdón en nuestra enmienda

que han sido recogidos en la enmienda de transacción y por eso la hemos apoyado queríamos que este

que contar con el acuerdo con la participación de todas lasinstituciones

a través de eudel diputaciones y gobierno vasco que se recoge y también como decía

exclusión como digo estos puntos se han recogido y por lo tanto vamos a apoyar

de transacción sin duda los efectos de la crisis económica están ahí los datosestán ahí y los gobiernos las instituciones las administraciones públicas competentes se tienen que poner manos a la obra y en este sentido creemos que es muy oportuno hacer un plan

a la vez que como digo se contemplen medidas dirigidas a la reinserción a la formación

tenemos las mencionadas leyes de garantías de ingresos y de servicios sociales aprobadas por amplia mayoría debiendo hacer especial mención

fuera de los umbrales de la pobreza tal y como algunos otros

además contamos con el resto de servicios y recursos de promoción del empleo y la actividad económica que hemos ido construyendo entre todos partidos e instituciones lo cual

fuera de él el informe sobre distribución de la renta de octubre elaborado por el departamento de hacienda del gobierno vasco destaca que euskadi está al nivel de los países con una distribución más igualitaria de europa y

el sistema de servicios sociales y de garantía de ingresos del que nos hemos dotado han contribuido a ello entre mil novecientos ochenta y seis y dos mil ocho

logro que se mantiene después de cuatro años de crisis económica con un índice solo mejorado por suecia hau esanda argi dago

el compromiso y la implicación de todos los agentes públicos y privados con responsabilidades y actividades en un determinado territorio es una condición necesaria

y para luchar contra la pobreza y la exclusión social entendemos que los ayuntamientos y diputaciones afectadas tendrán que participar en el diseño financiación

contra la pobreza y la exclusión social que se impulsa una participación social plena en este tipo de actuaciones no solo es recomendable como práctica general sino que a la hora de abordar planes integrales de intervención en un territorio concreto se demuestra absolutamente necesaria gure ustez

egon beharko duten martxan al objeto de intervenir con carácter urgente en aquellas zonas más desfavorecidas y necesitadas durante el periodo de elaboración de las propuestas el gobierno vasco priorizará las actuaciones contempladas en el programa de reactivación del empleo así como las distintas medidas vinculadas a las políticas sociales

en parte las negativas consecuencias relativas a la pobreza y la exclusión social en las zonas identificadas como objetivos de intervención proposamena

gracias de nuevo presidente andrea no tenía idea de salir pero sí voy a salir porque

es bueno señora blanco aquí en los ayuntamientos y también en las diputaciones y muchas veces como es este caso son temas que nos interrelacionan y claro señora blanco quien esté

de culpa que tira la primera piedra se dice pues así es

en el que yo creo que sí tengo razón y cuando le digo que tengo razón es porque ustedes gobiernan en los ayuntamientos y en la diputación foral de guipúzcoa y ustedes también toman medidas y a veces esas medidas

no sé si ustedes les llaman de otra manera pero se pueden llamar recortes y le quiero decir una cosa afectan a las personas y de qué manera al punto de que a esas personas su poder adquisitivo le disminuye tanto que les deja en una situación de pobreza y de exclusión social y ahí es donde entrarán en estos planes especiales

que se ha presentado no son las personas mayores en este momento las más afectadas son precisamente personas en edades mucho más jóvenes y también la infancia

antes he dado los datos y creo porque así me lo han apuntado que lo he dicho mal

cuando yo le he hecho referencia a algo es porque estoy en ese ayuntamiento y es un tema que me ha chocado profundamente porque además lo hace un partido abertzale y de izquierdas

han hecho un acuerdo en el que modifican los alquileres de viviendas sociales exactamente siete y le voy a decir un caso para que entienda

pagaba noventa y cinco euros de renta en una vivienda de alquiler social sabe cuánto bildu le va a cobrar ahora doscientos veinticuatro veinte el veinticinco coma setenta y seis

pero estas cosas son las que no se tienen que dar gobierne bildu

o si algún día gobierno upyd estas cosas no se pueden dar y estas son las cosas

en el ámbito de la pobreza y la exclusión social y se comprometa a implementar medidas eficaces pues ustedes lo que tienen que hacer en este ayuntamiento recular y corregir esto y por mi parte vuelvo a remitirme al acuerdo que creo que es

berriro le veo muy empeñada señora sarasua en volver a discutir sobre este tema si ya lo han debatido ustedes en el ayuntamiento no sé

lo que sí puedo entender es que le cueste que le cueste admitir que lo que hizo su gobierno lo que hizo el señor lópez con la renta de garantía de ingresos es un recorte eso lo entiendo

en la enmienda eso lo entiendo hay cosas que se nos escapan resulta que hace poco hemos tenido un debate sobre las ayudas de emergencia social

para ampliar la partida de este año ayer el señor consejero en la comisión nos admite que

es un recorte nos lo admitió y se ponía en disposición además de intentar solucionarlo en cuanto pudiesen también nos admitió que si en sus manos estuviera y si hubiera recursos económicos se ampliaría la partida de este año

todo eso lo escuchamos entonces cuando escuchamos todo eso y ahora hablamos de un plan de un plan nos preguntamos de qué se va a dotar ese plan de papel de aire si no hay dinero

cómo se puede hacer un plan para qué porque hay que dotarlo económicamente y si hay dinero pues nosotros y nosotras de verdad preferimos que se utilice para mantener y fortalecer el sistema que tenemos porque nos parece que lo que se está haciendo es parchear

que no se va a cumplir va a ser una declaración de buenas intenciones

mencionar otra de las cosas que sí que dijo el señor consejero que fue que siendo un derecho subjetivo

en los presupuestos no era suficiente tendría y sería ampliable ese pequeño detalle lo ha omitido y respecto al plan no sé si ha escuchado lo que yo decía en mi primera intervención pero decía que habría que hablarlo entre las diferentes instituciones

la financiación que correspondía a cada una de ellas los plazos etcétera por lo tanto yo creo que todo eso está previsto y se hará conjuntamente entre todos los agentes que van a participar en el mismo eta azken batean

mila esker presidente andrea muchas gracias señorías buenos días a todos

por lo obvio que resultan las conclusiones y en este caso además porque

mayoritario en torno a una enmienda de transacción que seguro que les están repartiendo o les van a repartir en breve

tantas décadas de terrorismo en euskadi tienen diversas caras pero una misma conclusión y es que tenemos que aprender de los errores

en los aciertos la consecuencia más terrible del terrorismo son sus víctimas directas quienes fueron asesinados quienes sufrieron en sus propias carnes la violencia y el terrorismo totalitario

permanece su memoria entre nosotros porque sabemos que una sociedad no puede ni debe olvidar a quienes representan aquello que el terrorismo quiso derrotar a través del asesinato

de sus víctimas que es el estado de derecho pero el terrorismo en sus diversas manifestaciones e intensidad ha dejado en nuestra tierra más consecuencias

la convivencia democrática en euskadi ha sido más un sueño que una realidad mientras ciudadanos de nuestro entorno homologaban su convivencia

aquí la política la discrepancia la vida ha estado condicionada por el miedo mientras la inmensa mayoría de vascos

conforme a las reglas del juego democrático construir una sociedad democrática una parte de nuestra misma sociedad decidió

de la amenaza y el terrorismo una forma de vida

y condicionaron nuestros espacios sociales pervirtieron el debate propagaron el odio e hicieron todo lo que estuvo en su mano para anular

de esta manera mientras eta asesinaba una parte de la sociedad justificaba esos asesinatos

una parte de la política le proporcionaba una justificación también política y de esta manera el odio se fue propagando el odio se fue consolidando y toda una generación de vascos nacidos

en democracia creció con la convicción de que amenazar de que insultar

tenía alguna justificación y hoy

no hemos conseguido su disolución que llegará porque

nos queda también el inmenso reto de derrotar el odio

la impunidad pero tenemos que derrotar y esa es nuestra inmensa responsabilidad hoy esa cultura

que justifica que cuando algo no gusta es insultado esa cultura política que cuando algo no se comparte es amenazado el estado de derecho se prestigia también rechazando los comportamientos que no tienen encaje y no tienen justificación alguna en democracia

está motivada porque como ustedes saben el pasado día cuatro de octubre un grupo de personas se manifestó ante la sede del partido popular de gipuzkoa

a quienes allí estaban precintaron la entrada impidiendo

e impidiendo también la salida de personas esto es lo que hicieron en la sede del partido popular de gipuzkoa pero no solo hicieron esto insultaron

y amenazaron demostraron que desgraciadamente aún hoy día hay quienes están dispuestos a hacer estas cosas

hay quienes están dispuestos a utilizar la intimidación para supuestamente defender una posición política o cualquier reivindicación

violentaron de una manera intolerable la actividad de un partido político

y preocupación lo peor de nuestra historia reciente volvió a manifestarse lamentablemente lo que creíamos que eran actitudes del pasado

esta proposición no de ley yo creo que el acuerdo de transacción lo refleja también fielmente pretende poner pie en pared en defensa

y en contra que es casi tan importante

de la amenaza e intimidación en democracia en nuestro estado de derecho señorías voy terminando ya no puede haber

no puede haber en democracia un resquicio para la amenaza para el insulto para la intimidación nuestra sociedad debe de tener a nuestro juicio

sólidos sobre los que construir un futuro inmunizado de violencia inmunizado de odio todavía queda mucho odio en esta sociedad es cierto

al discrepante no que discrepa que odia hasta el punto de estar dispuesto a amenazar

y esa es nuestra gran tarea porque nuestra tarea ha sido acabar con el terrorismo y hemos acabado pero ahora nos queda acabar con una de las consecuencias también no la más terrible pero

otra de las consecuencias del terrorismo que es el odio y la utilización de la amenaza y la intimidación en democracia yo quiero agradecer muy especialmente al partido socialista y al partido nacionalista vasco la disposición para llegar a un acuerdo de transacción y agradecer también a upyd

falta zitzaizun gauza bakarra da cómo están ustedes horrekin bukatzea

gracias señora presidenta señorías los socialistas siempre y en todo momento nos hemos pronunciado en contra de cualquier acto de terrorismo

de todos los actos de coacción amenazas chantajes

y las libertades de la ciudadanía siempre hemos estado en primera línea defendiendo

la pluralidad las reglas democráticas que nos hemos dado luchando

que daban amparo justificación y apoyo al terrorismo para intentar imponer un proyecto totalitario al conjunto de la sociedad vasca por esta firmeza por esta actitud por estar

las reglas de juego democráticas y el autogobierno hemos pagado un alto precio sufrimos asesinatos atentados

y por esa razón ahora que hemos acabado definitivamente con las actividades terroristas tenemos que seguir mostrando nuestro rechazo

intolerables de intimidación y acoso que todavía desgraciadamente se producen en nuestra sociedad y por eso precisamente en coherencia con nuestra historia

tenemos que condenar y rechazar los actos de intimidación y acoso que sufrió el partido popular en su sede de san sebastián y pedimos a esta cámara así lo hacemos en la enmienda transaccional que hemos firmado con el partido nacionalista vasco y con el partido popular que esta cámara rechace esas prácticas que deberían haber quedado para siempre en el pasado más negro y más macabro de la historia de nuestro país y

hoy aquí quite importancia a lo que fue un acto de intimidación

incluso de su intervención se puede desprender que las justifica

porque son absolutamente rechazables y especialmente usted debería

y segundo reclamar a sus compañeros de bancada

una vez más se lo diré que sean coherentes con el acta fundacional de ese partido

si lo fueran no tendrían que tener ningún inconveniente para votar la enmienda transaccional que hemos firmado partido nacionalista vasco partido popular y partido socialista de euskadi

que el acta fundacional de sortu dice que sus militantes

al rechazo firme e inequívoco de todos los actos de violencia de terrorismo y también

provoquen actos de violencia o de terrorismo que rechazan cualquier clase de convivencia política organizativa con la violencia

y con respeto a las reglas de juego que en cada momento estén vigentes por eso

todo eh bildu su grupo parlamentario sean coherente con este compromiso y por supuesto que el resto de los partidos que forman parte de la coalición sean coherentes con su historia porque seguramente si lo hacen no tendrían que tener ningún inconveniente insisto

a un partido político como el partido popular en san sebastián si lo hacen no tendrán que tener ningún inconveniente en rechazar todas las vulneraciones de derechos humanos incluidas también

reciente si lo hacen además seguramente estarán dando un paso importante para

construirlo juntos sobre valores éticos y democráticos básicos

democráticos de pluralidad en definitiva estarán dando un paso muy importante para que podamos construir la convivencia

cuando décimos que rechazamos firme e inequívocamente evidentemente estamos hablando de una terminología concreta que ha supuesto y debe suponer un avance pero más allá de la terminología yo creo que lo que es realmente estructural en ese posicionamiento

es la ruptura con el pasado la ruptura inequívoca no solamente orgánica sino con todos los comportamientos

en esa transición que necesariamente vamos a tener que consolidar en la dirección de una convivencia pacífica

y cuando estamos hablando de respeto a los derechos humanos de todas las personas también estamos hablando del derecho a la libre expresión y también al derecho a la manifestación

importante que desarrollar y décimos que rechazamos firme e inequívocamente actos de intimidación ante organizaciones políticas y se define actos de intimidación porque no es una simple manifestación

respeto a los derechos de las personas que en ese momento están y a las personas que están vinculadas con ese proyecto yo creo que por algo tenemos que empezar y yo creo que es una base

hay que implementar o añadir

porque los tiempos

de derechos se estaban produciendo sistemáticamente también van a requerir de nuevos comportamientos de nuevas formas

una evolución que necesariamente se tiene que producir esaten denean

sí gracias presidenta obviamente nosotros íbamos

presentar ninguna enmienda de totalidad porque compartíamos lo expuesto en esa iniciativa planteada por el grupo popular estábamos de acuerdo

a las personas directamente afectadas estábamos de acuerdo con expresar la preocupación ante la existencia de actos de intolerancia

ideológica y conductas antidemocráticas que solo buscan erosionar la convivencia y la democracia actos no lo olvidemos porque creo que esto es importante actos que pretenden sobre todo presionar a los partidos políticos democráticos condicionarlos y corregir

para adecuarlas a los postulados de los atacantes y a los postulados de quienes no creen en la democracia de hecho esta ha sido básicamente la historia de eta atacar a los partidos políticos democráticos para tratar de corregir sus posiciones para tratar de que aceptáramos

y de los servicios auxiliares de eta y obviamente estábamos de acuerdo con solicitar de todas las instituciones una especial sensibilidad y contundencia

es decir no teníamos obviamente ningún problema en votar a favor de la iniciativa original no es un tema menor conocemos la realidad vivida

los demócratas en el país vasco durante las últimas décadas amenazas directas e indirectas extorsión chantaje secuestros

violencia de persecución atentados asesinatos y todos estos hechos protagonizados por eta y por los servicios auxiliares de eta

y efectivamente en fin los asesinatos ocurridos las ochocientos cincuenta personas asesinadas durante todos este tiempo puede que haya quien incluso aunque no lo diga en voz alta pueda llegar a pensar que este en concreto que debatimos hoy es un tema menor y no lo es en absoluto estamos hablando en definitiva de los más básicos principios democráticos de la libertad de pensamiento de la libertad ideológica

en concreto también lo es hechos que demuestran que las actitudes

y que se mantiene el discurso del odio y que se mantiene la cultura de la violencia en una parte de la sociedad vasca y por eso digo que no es un tema menor

y porque sigue viva una banda terrorista amenazante y porque hay un partido legal pero dispuesto a seguir defendiendo la historia criminal de eta

mucho peores siguen siendo justificados por determinados representantes políticos en concreto los representantes de eh bildu es por lo que es necesario que

y es precisamente lo que no es la enmienda de totalidad presentada por eh bildu señor urizar ni su enmienda hoy presentada ni su discurso ni sus habituales actitudes ni sus habituales declaraciones ni sus hechos al fin y al cabo

ustedes siguen sin condenar a eta y siguen sin exigir a eta su disolución definitiva e incondicional al fin y al cabo señor urizar y los que se sientan junto a usted ustedes han apoyado históricamente hechos semejantes al que hoy se denuncia me refiero a la batasuna de toda la vida y a los representantes de eh bildu que siguen sin condenar a eta hechos como este

y extorsiones y secuestros por eso les interpelamos directamente a ustedes porque para entendernos quienes llevaron a cabo estos hechos o este hecho en concreto son los suyos los que les votan a ustedes los que se sienten representados por ustedes los que se sienten legitimados por su discurso el discurso que fomenta

si no recuerdo mal días después de que uno de ustedes insultará aquí a un parlamentario que pertenece precisamente al partido político que días después y esto es importante decirlo es decir los que cometieron este hecho

son los suyos son los que les votan a ustedes y por eso les interpelamos a ustedes porque y cuando digo nosotros digo los demócratas no hemos apoyado nunca ni apoyamos hechos semejantes mientras que ustedes sí y por eso puede

votación en la que ustedes vuelvan otra vez a quedarse solos y no vayan a votar esta enmienda de transacción que han firmado el grupo

y el grupo socialistas en fin habitualmente ustedes se quejan de que un servidor

o de que les acuse de apoyar hechos como el que hoy se denuncia

como los servicios auxiliares de eta en fin aquí tienen una nueva oportunidad para demostrar que pueden empezar a dejar de serlo a dejar de ser

votando esta transaccional que el resto de partidos políticos democráticos vamos a apoyar veremos en todo caso cuál es la votación definitiva

nosotros podemos mantener ese discurso de acusarles a ustedes de lo que realmente son los servicios auxiliares de eta

la realidad señor urizar es que hace un tiempo antes de que usted perteneciera a la coalición bildu este texto lo hubiera aprobado eusko alkartasuna condenaba a eta

hace un tiempo usted hubiera apoyado hubiera votado a favor de esta enmienda de transacción los que pertenecen a aralar

también hubieran respaldo este texto también

aunque el señor matute que no está y vuelve también

lo hubieran aprobado la realidad es que por mucho que se rían la triste realidad es que han sido fagocitados por el discurso de la izquierda abertzale tradicional

que no solo se negaba a condenar a eta sino que justificaba políticamente la existencia del terrorismo

a condenar actos de intimidación y de violencia sino que justificaba políticamente los actos de intimidación y de violencia no han arrastrado ustedes a la izquierda abertzale la izquierda abertzale les ha fagocitado a ustedes y han retrocedido como un cangrejo

si es que les preocupa en algo porque el señor matute ha votado en este parlamento en otras ocasiones condenar el terrorismo y hoy no ustedes

también y ahora no claro usted minimiza y es verdad que alguien podría minimizar viendo las fotos y conociendo los insultos que ahí se profirieron alguien podría minimizar efectivamente lo que paso

eso que decía usted de aquello no pasó de pegar carteles y pegatinas entonces qué hacemos damos por bueno

damos por bueno que se intimide porque bueno es una intimidación conocemos perfectamente tenemos

de qué supone la escalada que proporciona la inacción

a parar la banalización del mal la banalización de la amenaza la banalización del insulto que deriva

porque si no paramos si no ponemos pie en pared al totalitarismo desde el origen

y asesina además de que la sociedad está anestesiada y además de que la sociedad ya no le preocupa tanto

es muy complicado porque su lógica es si les insultan como en este parlamento

acepten que les insulten si les amenazan si les intimidan en su sede

cállense sigan permitiendo que les insulten y que les amenacen

éramos también nosotros los responsables ese discurso es inaceptable

inaceptable también que no podemos volver a permitir los vascos que se instaure en nuestra sociedad

y no nos enreden señor urizar el problema lo tienen ustedes

de la que son incapaces de salir pero que solo ustedes son capaces de solucionar y solo ustedes pueden solucionar pertenecen a una cultura política que se encargó de proyectar la idea amenazar estaba justificado de que manifestarse delante de las sedes de los partidos políticos discrepantes tenía una justificación

en democracia y ahora de la noche a la mañana pretenden que nos olvidemos

toda esa cultura de odio que ustedes han propagado políticamente ahora tienen que corregirla ustedes ustedes tienen que decirles a sus bases

tantos años que amenazar e insultar al discrepante estaba bien

pero son ustedes los que lo tienen que hacer nosotros no les podemos hacer también este trabajo porque en su día nos enfrentamos al totalitarismo y al terror en su día compañeros nuestros cayeron en su día hicimos un esfuerzo por sustentar el estado de derecho y ahora lo que no pueden pretender es que nosotros también les hagamos el trabajo háganse mayores democráticamente

díganles a esos que se manifiestan en la sede del partido popular y que impiden la entrada y la salida que esto no está bien que es condenable que en democracia no se puede tolerar

como ya hemos sabido que sucede cuando no se para a los totalitarios desde el origen

una vez más será suya y solo suya muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eh bildu taldearen ordezkaria den

señor ares yo creo que la última vez que

que sobre mi coherencia personal con la historia

que ni la mente porque yo creo que si la ponemos en comparación las dudas no van a salir de mi parte eso lo primero

una oportunidad a la hora de firmar la transaccional

lo que yo tengo claro es que no voy hacer el juego al partido popular

porque de nuevo se ha perdido la oportunidad por parte suya y por parte del resto de condenar

eso no son ataques o eso no es coacción coacción armada además en uno de los casos

siempre por parte del estado y sus herramientas eso no eso no se puede condenar bakoitzak berea egin dezala

la verdad es que está bien saber qué hubiera hecho el vecino porque desde luego quizás nos tiene que dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas o lo intenta pero no lo va a conseguir porque no tiene para darnos las lecciones ya le he dicho antes en un momento que hemos estado hablando

sobre su sede que si estábamos hablando de su sede podíamos hablar de la de eusko alkartasuna podíamos hablar también

que nosotros entendíamos que aquí tenía que haber un compromiso concreto más allá de los casos concretos un compromiso más general

y hablando del totalitarismo de la banalización yo también tengo un par de fotos aquí las puedo sacar no no las voy a sacar

fotos del brazo en alto fotos del aguilucho en

eso es lo que ustedes también consiguen cuando banalizan entre otras cosas el franquismo cuando banalizan los cuarenta años de dictadura claro y es que ustedes alimentan a ese pájaro y ustedes también lo están sufriendo porque cuando fueron la última vez a madrid a la manifestación de las víctimas convocada por la avt

ustedes alimentan a eso y luego nos hablan a nosotros de totalitarismo y nos

ustedes son el vivo ejemplo de lo que pasa con las políticas y cuando se alimenta el monstruo

algunos años más en política y le emplazo a que se relea las actas de este parlamento a que revise los videos a que vea los medios de comunicación

audiovisuales para que compruebe en cuantas ocasiones los responsables de su partido en el pasado se manifestaron con toda claridad en contra de todos los actos de violencia condenaban rechazaban todos los actos de violencia de intimidación

de chantaje comprendo que a usted le moleste que le recordemos esto pero yo le emplazo a que lo vea porque

que no mantenga esa misma posición y en todo caso qué problema tienen con la enmienda transaccional que hemos firmado partido popular pnv y partido socialista que dice cosas

a los actos de intimidación realizados ante las sedes de organizaciones políticas y es verdad que después dice en especial a la referida al partido popular o que problema tienen que el parlamento diga que la libertad la paz la convivencia que exige la sociedad vasca

así como los derechos y libertades de todas las personas qué problema tiene usted o tienen los parlamentarios de aralar o de alternatiba para votar esto y ser coherentes con su pasado comprenderá que le digamos que

y que poca coherencia se tiene con el pasado cuando estas cosas a ustedes les crean problemas para votarlas y comprenderán también sus compañeros de bancada

que les recordemos que ellos se han comprometido y lo haré muchas veces hasta que

a recordarles que dicen que desarrollarán su actividad desde rechazo a la violencia

cualquiera que sea su origen y naturaleza subrayo cualquiera que sea su origen o naturaleza

y hoy fíjense ni siquiera en la enmienda transaccional hemos puesto condena

cuesta mucho asumir hemos puesto rechazo por lo tanto les emplazo también qué problema tienen en asumir el rechazo a la coacción a la amenaza a la violencia a la vulneración

explíquenlo porque sino serán absolutamente incoherentes con lo que se han comprometido y lo que es peor en actitudes que creíamos superadas y

desgraciadamente en euskadi la historia está plagada

después se amenazan ojalá nunca vuelva a ocurrir pero después esas amenazas y esas coacciones se materializaban en actos mucho más graves de atentados de asesinatos o lo que es más de quemas de locales de otros partidos políticos nosotros no queremos volver a ese pasado

con que aquellos que materializan esos comportamientos absolutamente inaceptables de coacciones y amenazas

el texto ofrecido esta mañana por lo menos por parte de quien tiene la representación de veintisiete de los parlamentarios

iba en esa línea de conciliar posiciones que si tratábamos por lo menos incluso

los textos evidentemente todos los textos son mejorables pero estaba desde luego despojado el texto de esa magia de las palabras

de los discursos que necesariamente al parecer tenemos que verbalizar aquí iba concretamente

a rechazar los actos de intimidación ante las sedes de las organizaciones políticas es verdad que tiene este tema un protagonismo especial porque la iniciativa es del partido popular por eso entre comas se mete

y no creo que ninguna de las formaciones políticas o grupos parlamentarios o parlamentarios

tengamos reserva alguna para rechazar actos de intimidación cada uno lo que entienda por intimidación dónde está el campo de la libre expresión no yo intimidación como se está asintiendo por lo menos la interrogación pues hemos conocido de todo no es que tenga que traer aquí un book de fotos pero intimidar significa pintar las sedes acceder a las mismas embadurnar zarandear a los dueños

hizo eso antes ahora se pregunta qué es lo que puede hacer dónde tiene los límites pues alguien que interprete bien los estatutos de sortu lo que debe decir

es decir que eso tampoco protestar sí pero intimidar y coaccionar no y ahí está el límite

pedagoguización o progresión en la política lo hemos intentado

en la transacción obsérvese el texto propuesto qué proyección ha tenido en la transacción qué es lo que ha desaparecido o se ha incorporado sin más

lo hemos intentado y ya ven que efectivamente por mucho que ustedes lo intenten no logran que eh bildu vote a favor de una transaccional

es un acuerdo de mínimos ni así han conseguido ni así van a conseguir que eh bildu se sume a un acuerdo que es en fin democrático perfectamente democrático y que cualquier partido democrático cualquier parlamentario democrático votaría sin ningún tipo de problema porque es evidente

de mínimos es lo mínimo que cualquier político democrático puede apoyar de hecho en nuestra opinión se queda corta la votaremos la apoyaremos

y ya ven ustedes que en fin ni siquiera rebajando los textos logran que estos señores se suman decía usted que han tratado de conciliar posiciones las posiciones son muy claras o se defiende la democracia o se defienden los postulados democráticos o se defiende la no violencia o se defiende justo lo contrario y estos señores no quieren dar el paso de condenar el terrorismo y condenar la violencia por lo tanto pueden ustedes hacer todos los esfuerzos que quieran

los discursos conciliar los textos rebajar las exigencias que finalmente estos señores no se van a sumar a un texto que es de sentido común ya digo es una transaccional o un acuerdo de mínimos se plantea

la paz y la convivencia que exige la sociedad vasca tiene que construirse sin terrorismo

respetando las reglas de juego democráticas que nos hemos dado así como los derechos y libertades de todas las personas y se manifiesta el rechazo firme e inequívoco ni siquiera la condena ustedes han preferido quitar la palabra condena para incluir

inequívoco de los actos de intimidación realizados ante las sedes de organizaciones políticas pues bien ni siquiera este texto van a apoyarlo ni siquiera este texto y en nuestra opinión quien no vota a favor de esto se sitúa fuera de la democracia y fuera de la ley digan lo que digan los estatutos de sortu a los que habitualmente usted y ustedes hacen

no van a apoyar una enmienda que es perfectamente razonable y ciertamente insisto es una transaccional que en nuestra opinión se queda

se podían haber dicho muchas más cosas se podían haber dicho algunas cosas más en concreto se podía haber hecho referencia a la aplicación rigurosa de la ley

recoger ahí la aplicación rigurosa de la ley incluida la ley de partidos y mostrar la máxima contundencia

la sensibilidad democrática pues ni siquiera estos ni siquiera este texto ni siquiera

han preferido ustedes recoger por qué por lo tanto no se ha incluido esto por qué no se ha hecho una referencia concreta a la ley a la aplicación rigurosa de la ley

condena por qué creo que no es aconsejable que los partidos políticos democráticos rebajemos continuamente nuestro listón si tenemos las cosas claras

y es de mínimos insisto en que se queda corta en las próximas ocasiones hagan ustedes el favor de referirse al respeto a la legalidad vigente y a condenar este hecho o hechos semejantes no bajen el listón de la democracia no bajen de los partidos políticos democráticos en fin que eh bildu no apoye este texto creo que demuestra su miseria moral y que haya quien les vote

demuestra que parte de la sociedad vasca tiene una problema ético de primera magnitud y esto hay que volver y que ustedes no hayan incluido un tercer párrafo o que el partido nacionalista vasco no haya querido incluir un tercer párrafo o que ustedes no hayan querido incluir el verbo condenar

incluir el respeto a la legalidad vigente evidencia también que hay otro problema añadido en parte al menos de algunos partidos políticos democráticos sean ustedes exigentes

exigencias ya digo y para terminar una enmienda de transacción creo que es de mínimos debería haber sido mucho más contundente pero en todo caso nosotros lógicamente